buenos días egun on en el debate de la interpelación

tuviera un espíritu constructivo y de ver qué esfuerzos realizaba el gobierno para ir neutralizando actitudes como las que se describen en al auto del juzgado de instrucción núm cuatro de vitoria gasteiz en relación

fue y es conocido como el caso miñano caso kataia caso de miguel ha tenido otras denominaciones el auto describe unas situaciones y comportamientos ligados a la comisión de determinados delitos prevaricación malversación de caudales públicos cohecho

tráfico de influencias y unos cuantos más que tienen algunos de ellos incidencia y sustento en actuaciones ilícitas en el marco de la actuación de personas

de diferentes administraciones públicas vascas y de sus sociedades públicas formas de proceder que afectaban al dinero público y que se enmarcaban en las relaciones de responsables políticos con empresas privadas y particulares fundamentalmente incluso con empresas

está claro que hoy estamos a la espera del definitivo juicio según ha decidido el juez que ha instruido la causa pero también

también lo ha hecho para cómo se debe y se puede atajar desde los controles políticos y administrativos que estas circunstancias no se vuelvan a producir o que sea mucho más difícil que se produzcan es cierto que hablamos de responsabilidades

pero no es menos cierto que pueden darse pasos y adoptarse medidas para que se puedan neutralizar esos comportamientos descritos por el juez como dije en la interpelación yo no voy a entrar en el terreno de los nombres o de los cargos sino en lo relativo a las actuaciones

esfuerzos de control posteriores queremos conocer si el gobierno vasco se ha tomado en serio las recomendaciones de la comisión de investigación parlamentaria

en sesión plenaria de esta cámara celebrada el día diez de mayo

el pasado día el consejero erkoreka dijo que estaban trabajando y lo queremos comprobar no voy a recordar los trabajos de la comisión ahí está el dictamen

realizaba una serie de recomendaciones al gobierno este pleno realizaba una serie de recomendaciones al gobierno

de los trabajos de las comisiones de investigación por lo menos en la práctica parlamentaria

mejorar procedimientos y controles en determinados aspectos relativos a contratos del sector público a contratos menores a fraccionamiento de contratos a oficina

a publicidad suficiente a información en la página web del gobierno vasco

y sus intereses concurrentes a la habilitación a la oficina de control económico para verificar la presentación de los trabajos realizados

como adjudicadores una amplia lista de recomendaciones y de actuaciones que se instaba al gobierno vasco a actuaciones concretas

políticos de la administración general del país vasco y de otras administraciones pero en concreto las

como el de cultura industria en sociedades públicas como el parque

ya nos dijo que se estaba trabajando en el desarrollo de esas recomendaciones en la sustanciación de la interpelación

nosotros es donde queremos para comprobarlo plantear la moción que ustedes conocen algo muy grave ha pasado con el caso miñano o con el caso de miguel y la sociedad quiere

ante estos casos que se reaccione contundentemente ante estos casos

ha supuesto un mazazo en muchos ámbitos de actuación pública y hay que reaccionar

en ese sentido por eso sustanciada en el pleno celebrado

nosotros desde el grupo parlamentario popular vasco solicitamos el respaldo de la cámara para la siguiente moción es que el parlamento inste al gobierno vasco a que realice en el plazo del actual periodo de sesiones un informe sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones dirigidas al ejecutivo que figuran en el dictamen de la comisión de investigación de presuntas irregularidades en los departamentos de cultura e industria y sobre el

aprobado por el pleno de la cámara el diez de mayo de dos mil doce esa es la moción que nosotros presentamos creo que es un trabajo que

el consejero ha dicho que ya estaba avanzado así que en ese sentido yo creo que hay tiempo suficiente y en relación con las enmiendas presentadas

constructivas yo entiendo además que la del señor maneiro que comparto al cien por ciento merece aparte y me gustaría que el propio representante de upyd lo plantease en forma de proposición no de ley o como él estimase oportuno yo creo que requiere un debate específico en relación con actividades con actuaciones públicas lamentables en relación con

judicial y en ese sentido yo creo que sí que merece un debate aparte pero yo creo que el objeto de esta moción y de esta iniciativa es precisamente tener información del gobierno sobre esas actuaciones concretas y ya le digo que yo comparto al cien por ciento

su enmienda de totalidad pero en cualquier caso creo que nos tenemos que centrar en lo que dice la moción concreta

está la enmienda del partido nacionalista vasco que lo que quiere es alargar el plazo de presentación del informe algo que entiendo dilataría

y sería perjudicial a los efectos de que el parlamento tuviera que tomar alguna iniciativa es decir nosotros entendemos que es bueno que esté en este periodo de sesiones el informe

tengamos el tiempo suficiente y yo creo que además el trabajo tendría que estar ya hecho son varios años son tres años de trabajo en relación con este tema o sea que por lo menos el informe de situación de las recomendaciones yo creo que bien puede estar

el planteamiento yo creo que ese es el tema la enmienda de totalidad del partido nacionalista vasco creo que no es

porque el trabajo parlamentario se vería dilatado y además lo que queremos es identificar lo que se ha hecho en orden al cumplimiento y

debe requerir poco tiempo nada más muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

lehendakari la moción planteada por el señor carmelo barrio está bien pero es claramente insuficiente en nuestra opinión

a que realice en el plazo del actual periodo de sesiones un informe sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas por este parlamento hace tres años y creo que esto es poca cosa conociendo lo que conocemos a día de hoy sabiendo lo que ha ocurrido

han ocurrido y habiendo conocido también y habiendo escuchado en concreto algunas declaraciones absolutamente lamentables e inaceptables realizadas por altos dirigentes del partido nacionalista vasco en relación a esta cuestión durante los últimos días y yo considero que este parlamento

la suficiente agilidad como para poder debatir asuntos que estén de plena actualidad por esto digo que esta moción está bien

creo que a día de hoy en este parlamento deberíamos estar en disposición

de decir algo más que únicamente pedir al gobierno que presente ese informe antes del treinta de junio creo que estaríamos en disposición de decir y es lo que nosotros planteamos que este parlamento diga hoy podríamos efectivamente retirar la enmienda posponerla o presentar una iniciativa para

o del señor ortuzar y hablarlas dentro de mes y medio o dentro de dos meses o quizás después del verano pero me parece que tenemos la oportunidad

que habla sobre la cuestión declaraciones que se centran en esta cuestión sobre la que debatimos por lo tanto para qué vamos a posponer debates

la suficiente agilidad para poder debatir de asuntos de plena actualidad y las declaraciones realizadas por altos dirigentes del partido nacionalista vasco

impresentables y por lo tanto pido el voto de los grupos de la oposición para que puedan votar a favor de la enmienda presentada por upyd

claramente en contra de determinadas actuaciones corruptas o presuntamente corruptas creo que también estaríamos en disposición de poder hacerlo

creo que es de plena actualidad y por lo tanto la mantengo en relación a los hechos evidentemente no merece la pena hacer un repaso de los

todos los conocemos y sabemos la gravedad de los mismos lo cierto es que todo

cuando una empresaria abre la causa al denunciar que de miguel y otro dirigente del partido nacionalista vasco alavés aitor tellería la habían extorsionado para cobrarle una comisión por la adjudicación del contrato de ampliación del parque tecnológico

todo lo demás lo cierto es que el juez procesa a veintiséis personas por once delitos extraordinariamente graves en una trama de corrupción al parecer

o vinculada a personas relacionadas directamente con el partido nacionalista vasco y efectivamente los delitos son muy graves estamos hablando de prevaricación de omisión del deber de perseguir delitos de tráfico de influencias de blanqueo de capitales de malversación de caudales públicos de fraude a las administraciones públicas

a los funcionarios públicos de falsedad en documento público y o mercantil contra la hacienda pública o alteración de precios en concursos y subastas

como para que este parlamento se posicione se posicione muy claramente en contra de estas supuestas prácticas más allá de lo que finalmente diga la justicia y también se posicione claramente en contra de determinadas declaraciones realizadas por altos dirigentes del partido nacionalista vasco que no han tenido otro propósito que defender a los suyos y condicionar

de la justicia lo último que sabemos es que el juez del juzgado de instrucción número cuatro de vitoria ha desestimado los recursos presentados por quince de los veintiséis encausados de forma que ratifica su decisión de seguir el procedimiento

un auto anterior de fecha nueve de marzo el juez señala el objetivo de la presunta trama obtención de contratos públicos de forma irregular y cobro de comisiones ilegales si de esto se benefició el partido nacionalista vasco

pero parece obvio que estas personas se valieron de su destacada posición política

ilegalidades sobre si el partido nacionalista vasco sabía algo o no lo sabía no podemos afirmarlo pero en todo caso resulta difícil pensar que no lo sabía cuando muchas de estas personas estaban claramente vinculadas al partido nacionalista vasco pero en todo caso

tenían que haber dicho es que estas prácticas son en todo caso inaceptables esto es lo que tenían que haber dicho en lugar de decir lo que han venido diciendo durante los últimos días tanto

como el señor ortuzar el señor ortuzar dijo que la investigación podría tener un interesado impulso habló de maltrato al partido nacionalista vasco dijo que no se han dado todas las garantías procesales ha atacado al fiscal jefe de álava ha hablado de manipulación ha dicho que hay un interés de tirar piedras contra el tejado del país como si el país fuera el partido nacionalista vasco y por su parte el señor egibar ha hablado de que hay una intencionalidad para que el caso en vísperas electorales y a nosotros esto nos parece absolutamente lamentable y sobre esto también debería posicionarse hoy para qué esperar hoy este parlamento independientemente de la presunción de inocencia lo que necesitamos son políticos y representantes institucionales

inaceptables determinados comportamientos supuestamente corruptos

esto es lo que tenía que haber dicho el señor ortuzar esto tenía que haber dicho el señor lehendakari que estos comportamientos son absolutamente esto es lo que se tenía que haber dicho en lugar de hablar de la presunción de inocencia o tratar de presionar a la justicia se puede hablar de presunción de inocencia evidentemente que sí pero también se debería hablar de presunción de inocencia de la justicia en lugar de atacar los procedimientos judiciales y decir que lo que se pretende es al partido nacionalista vasco en fin estamos hablando por lo tanto de una trama de una presunta trama organizada de comisiones ilegales que afecta a una veintena de personas relacionadas con el partido nacionalista vasco y tenía que haber sido el propio partido nacionalista vasco el partido político más contundente y más beligerante contra este tipo de actuaciones y evidentemente exigir

todas las responsabilidades esto tenía que haber dicho más allá de la presunción de inocencia evidentemente el juez y la justicia hablarán

que lo que se pretende es atacar al partido nacionalista vasco en lugar de decir esto lo que se tenía que haber dicho es que estos comportamientos tienen que ser desterrados absolutamente y eso es lo que plantea nuestra enmienda creo que estamos a tiempo de poder debatir sobre ella para qué vamos a esperar mes mes y medio

por lo tanto mantengo nuestra enmienda de totalidad que me parece más clara más contundente más actual y que va más allá de la moción planteada
por el partido popular gracias eskerrik asko maneiro jauna

como no es precipitada la interpelación el dictamen dice que hay que empezar ya a trabajar ya empezar a trabajar ya mozioa ere

la presentación del informe me resulta sorprendente señor barrio por cierto en aquella interpelación que el señor barrio realizó

expuso una serie de medidas que en su opinión ya estaba tomando su gobierno y que en palabras textuales suyas estaban todas

guiadas por el espíritu de poner las bases para un gobierno más transparente en el que no haya espacio para corruptelas amiguismos ni espionajes

espionajes también en el título de la iniciativa de hoy aparece la palabra espionaje y sin embargo a algunos efectos por lo menos tres años no pasan en balde gorka maneiro dijo sic

constatar fehacientemente que se creó un burdo sistema de espionaje controlado por un diligente del pnv juanjo agirrezabala dijo

afirmar que dos agentes de la división antiterrorista colaboraron con el señor tellería para transmitirle información el propio karmelo barrio dijo

los responsables de una colaboración irregular para la transmisión de información

es del partido socialista dijo el espionaje a diferentes personas públicas ha sido parte de la investigación y esto es lo más grave para el sistema democrático yo considero que lo más grave para el sistema democrático es la frivolidad que lleva a algunos a poner en la picota pública a personas concretas y a sus familias para que luego resulten absueltas por una sentencia que dice que los indicios son de todo punto insuficientes

policial sino básicamente de cotilleo que era por cierto la tesis que nosotros defendíamos

egiten no cabe duda de que la acción humana siempre es perceptible cualquier procedimiento es mejorable tanto es así que seguro que no existe procedimiento perfecto

pero es evidente que el gobierno vasco está avanzando en materia de controles y sobre todo en materia de transparencia de hecho

al gobierno emitir el informe que la iniciativa del señor barrio pide al contrario

cuando el gobierno aporte el informe a la cámara que lo hará de hecho así lo hemos pedido nosotros como grupo parlamentario en nuestra enmienda aunque es cierto que

hace tres años acordó con el entonces gobernante partido socialista retrasar la presentación de aquel informe hasta el final del año dos mil doce pues tres años después

nos parecería lógico que llegara al mismo acuerdo con nosotros pero parece que no va a ser así además

el proyecto de ley de administraciones públicas que el gobierno ha presentado en esta cámara va bastante mas allá de la ley aprobada en madrid y después tenemos el otro tema

ha tratado que también aparece reflejada en una interpelación que se llevará a cabo mañana al lehendakari por parte del partido popular

se mueven en respecto al mismo tema entre comillas inaceptables declaraciones de destacados representantes del pnv contra las actuaciones de la justicia

tengo que decir que yo no creo que nadie nadie esté libre del pecado original y desde luego lo que no creo

como base del discurso político es más creo que el poder judicial en ocasiones se extralimita o se ha solido extralimitar y por poner algunos ejemplos

y hablo a título personal por supuesto que varios macro sumarios contra la izquierda abertzale

que las sentencias y los autos que se corresponden con el caso bateragune no son de recibo y yo creo que decir dar jaque mate podrá no gustar pero que no es delito por ejemplo y tengo que decir que como dijo

que en el auto de imputación hay párrafos y párrafos de copy paste del dictamen de la comisión de investigación claro que jueces por la democracia ha salido diciendo que no pasa nada que eso es así porque los miembros de la comisión eran expertos en derecho y hubo solo dos licenciados de derecho en aquella comisión de investigación una yo misma y certifico que de experta nada y otro el señor barrio

como para adivinar tres años antes literalmente con puntos y comas párrafos enteros del auto de imputación

yo lo denominaría adivino eso sí cuando se

varias veces denunciamos la afición esto también entre comillas que tenía el presidente de la comisión

en sede judicial con el fiscal y con el juez no sé si esto tendrá algo que ver con lo que estamos tratando y que un portavoz que jueces por la democracia salga diciendo que un copiar pegar es

voy a añadir esta frase a mi colección personal de eufemismos muy divertidos

las actuaciones de los jueces siempre son revisables por el propio poder judicial cierto solo que pasan los años y nos vamos poniendo viejos

quisiera comentar y ha dicho independientemente de la presunción de inocencia

que eso demuestra una baja calidad democrática que

los diferentes tribunales irán dictando sentencias y previamente investigando teniendo en cuenta o no los recursos que presenten los imputados

sentencias absolutorias también en este caso pero en cualquier caso

estoy todavía con los ojos a cuadros después de oír algunas cosas de la representante del pnv puedo quizás llegar a entender

lo que ya se me hace mucho más difícil de entender y además

acusaciones sobre la imparcialidad o no de la justicia verdad

que dentro de la cultura democrática está por supuesto el compartir o no sentencias judiciales pero está también

que es lo que están haciendo ustedes y criticar la actuación de la justicia cuando le parece que pueden hacer daño a su partido creo que esa cultura democrática

asentada en determinados representantes políticos en cualquier caso sobre lo que hoy nos ocupa

la moción presentada aunque solo sea porque pide algo

ni más ni menos y que se rinda cuentas de este cumplimiento algo que parece de lo más elemental de la lógica democrática y parlamentaria

como hemos dejado bien patente en la última comparecencia del secretario de relaciones con el parlamento ya nos había avisado por cierto el propio lehendakari a preguntas de nuestro grupo hace mes y medio ya nos dijo que él no desoía los mandatos parlamentarios pero que no los tomaba como tales

es decir lo cumpliría o no lo cumpliría a conveniencia eso es lo que ocurre también en este caso porque compartimos las explicaciones que dio el consejero erkoreka

creemos que hay que respetar los tiempos de la justicia y que hay que garantizar todos los derechos de las personas implicadas por supuesto pero en este caso hay una vertiente judicial

y hay hechos contrastados como el dinero público concedido a empresas que no pueden probar hasta la fecha que hayan realizado los servicios pagados

aquel dinero público que no cumpliera sus fines con independencia de la responsabilidad judicial

y ahí sí que discrepamos de lo que dijo el consejero hace mes y medio presumiendo de medidas de transparencia

porque como este mismo parlamento a instancias socialistas acaba de reprocharle al ejecutivo en esta legislatura se han dado no pasos adelante sino pasos atrás en el control precisamente de los contratos menores como acreditó este parlamento

y como parece que hay una mayoría de este parlamento que tampoco ve compromiso de transparencia suficiente en la ley de administración pública

de testar la verdadera voluntad y de la que tendremos ocasión de hablar la próxima semana la pasada legislatura sí se realizó un trabajo intenso y riguroso sobre el caso que nos ocupa

a unas conclusiones que fueron respaldadas por la gran mayoría de los parlamentarios de esta cámara y también por quienes ahora en esta legislatura nos sentamos en estos escaños

por la eficacia en la gestión de los dineros públicos y por la mejora en las políticas de transparencia

y cumplir lo que esta acuerda dentro del respeto a las normas vigentes solicitar algo tan básico tan elemental como el cumplimiento de lo que determina en este parlamento no debía ser objeto ni siquiera de discusión por parte de ningún grupo político en este caso

y esto ya está siendo norma en esta legislatura porque el gobierno ha constituido en su propia norma de funcionamiento y en la versión del lehendakari oír

pero no escuchar y desde luego cumplir solo aquello que le interesa y por eso no vamos a entrar en la asunción de responsabilidades judiciales porque eso corresponde

algo tan sencillo como lo que aquí se propone cumplir los mandatos parlamentarios y rendir cuentas de los mismos eskerrik asko pastor jauna

egun on guztioi corría el siete de marzo de dos mil diez cuando agentes de la ertzaintza detienen en sus domicilios a una serie de personas vinculadas al pnv alavés

realizadas en las contrataciones públicas mordidas que practicaban a través de una serie de empresas pantalla las personas detenidas con el paso del tiempo

las imputadas en el caso de miguel siendo el caso de corrupción más importante de la historia de araba

previa a la actual crisis el partido nacionalista vasco se ha visto salpicado de varios casos de corrupción casualmente

epsilon no parece casual que todos estos casos que se sucedían en araba no fuesen conocidos por el partido al que pertenecían todos los imputados en el caso de miguel de los casos más aún si algunos eran personas de la propia estructura del partido y salvo que se repita la estrategia del partido popular en el caso bárcenas

cosa que no realizó con ningún otro de los imputados parece que por lo menos cierto apoyo político por parte del partido existía si bien al honor a la verdad se podía hablar de dos maneras de ver el problema por un lado el presidente del ebb

del partido a los imputados y por otro lado la postura y defensa del pnv alavés y del propio egibar

no lo digo yo lo dice la hemeroteca del día treinta de julio del dos mil once gauza asko gertatu dira gaur arte

por un lado que no es un caso de financiación irregular y por otro lado que nada tiene que ver este caso con el pnv los casos de corrupción en el pnv deben ser

las múltiples excepciones que justifican la supuesta regla de la honradez en la gestión la verdad atendiéndonos a los hechos que han ocurrido es solamente una existió una comisión de investigación que dejó a las claras

desde las irregularidades señaladas se realizaron una serie de recomendaciones fueron aprobadas en pleno del parlamento y remitidas al gobierno de la anterior legislatura

y ha imputado a veintiséis personas relacionadas con el pnv

estos imputados han podido incurrir en once delitos entre ellos

y malversación de caudales públicos beraz errealitatea egoskor

agintariak izandakoak mientras que el lehendakari hablaba de respetar el acto del juez

no compartían su punto de vista y lo criticaban parece que el caso de miguel sí está relacionado con este partido hoy se nos presentan dos alternativas para votar

lo que se me hace raro es pedir al gobierno que cumpla con los mandatos del propio parlamento

aunque teniendo en cuenta que el informe que se solicita es para el final del actual periodo de sesiones y que es para conocer si se han cumplido o no las recomendación de la comisión de la investigación que el propio pnv

aunque ya sabemos la respuesta de dicho informe siendo sinceros cuál creen que es el nivel de cumplimiento de las recomendaciones el punto al que más importancia se le dio que era que el gobierno vasco recuperase el dinero público invertido no se ha hecho

la administración pública paga un dinero a empresas relacionadas con personas del pnv estas personas son señaladas políticamente

y la honorabilidad del propio partido se demuestra que aunque pueda ser legal es un chanchullo y un aprovechamiento ilícito del dinero público y al final las instituciones gobernadas por el pnv no reclaman la devolución de ese dinero dinero que por cierto se pierde en entramados de empresas y desaparece como por arte de magia

sea un paso previo interesante a pedir responsabilidades políticas al partido del gobierno y al propio gobierno en los departamentos señalados así que votaremos

el voto favorable a los que lo han anunciado yo le quisiera convencer al señor maneiro también de que lo haga a favor

ya lo he dicho pero pretendo yo una iniciativa

técnica para comprobar de la manera más pronta posible la actuación del gobierno y poder tomar iniciativas parlamentarias a la vista del informe

esta fase o esta dimensión política efectivamente crítica

de donde surge pero también técnica porque yo creo que es bueno que en junio tengamos ese informe lo estudiemos y podamos reaccionar podamos comprobarlo podamos ver el nivel de cumplimiento

y podamos reaccionar y podamos establecer iniciativas parlamentarias y a la vez también poder estudiar y analizar y debatir una iniciativa de las características de las que usted me propone si usted dice que no la va a presentar

su texto como proposición no de ley porque a mí me interesa ese debate me interesa me interesa porque tiene usted razón me interesa ese debate porque

el pnv no ha reaccionado bien el pnv no ha reaccionado democráticamente ante este caso no lo ha hecho

lo podemos comprobar y eso sí que lo podemos debatir porque ahí sí que entraríamos

que usted también analizase la dimensión técnica de esta iniciativa que yo planteo vuelvo a decir queremos analizar el tema de los contratos del sector público efectivamente en qué nivel se ha avanzado

la presentación de los trabajos realizados la actuación de los parques tecnológicos como adjudicatarios el análisis de las empresas invitadas y sus intereses

importantes aquí qué se ha avanzado en relación con la transparencia con los controles y con todas esas cuestiones que pedíamos y que este parlamento

inteligentes además esas recomendaciones claro que sí claro que sí le pedimos al gobierno

en qué se había avanzado pero bueno el gobierno se disolvió y lógicamente no pudo seguir trabajando en esas recomendaciones y si lo hacemos ahora precisamente al actual gobierno porque es nuestra obligación señora

no distraiga la atención señora arrizabalaga no distraiga la atención yo le ruego que se centre por favor en la iniciativa que yo he presentado después de la interpelación que yo mantuve

llevan ustedes este caso que mal llevan ustedes este caso

desde luego experto en derecho no soy sí soy licenciado en derecho pero experto desde luego que no así que en ese sentido téngalo por seguro pero insistencialista sí soy y desde luego

en todo lo que dije en la aprobación del dictamen

en cada momento de los sucesivos momentos que tuvo los trabajos de la comisión de investigación parlamentaria porque la verdad es que

opinamos y sobre esas analizamos y además

efectivamente quiero que el gobierno trabaje y quiero que el gobierno nos informe de lo que ha hecho en relación con esta cuestión y además usted ha dicho que no hay problema para presentar este informe pues que lo presente porque tiempo ya ha tenido efectivamente tres años para trabajar

facilitar también luego el trabajo del propio parlamento vasco mire señora

y agriamente y distrayendo la atención cuando son ustedes los que tenían que ser ejemplares

cuando son los que tenían que ser ejemplares no frivolizar no distraer la atención

además tenían que ser ejemplares por humildad por el pnv y el caso de miguel

de la separación de poderes de primero de democracia de primero de democracia ese reconocimiento y porque ustedes lideran el gobierno y la sociedad necesita referencias contundentes ante los delitos aunque lo cometan miembros del propio partido pero necesita referencias contundentes dónde está la autocrítica en el pnv esa autocritica que el lehendakari pide a los demás
dónde está muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

sí gracias presidenta vamos a ver la enmienda planteada por upyd es

el grupo popular está de acuerdo con la enmienda planteada por upyd y en los demás grupos también estarían dispuestos incluso a votarla o al menos de sus discursos entiendo que están de acuerdo con lo que aquí se plantea por qué no hacemos por lo tanto

de su moción con mi enmienda para una transaccional más completa podamos sacarla adelante hoy en lugar de dentro de mes y medio cuando

la moción consecuencia de interpelación que van a defender mañana precisamente sobre esta cuestión hombre si estamos en contra de las duplicidades eliminemos también las duplicidades parlamentarias para qué vamos a duplicar debates por qué no debatimos ya sobre lo que aquí proponemos este es el asunto para qué vamos a posponer

hace una semana a dentro de mes y medio para qué una duplicidad parlamentaria que no interesa más que al partido nacionalista en fin ya digo nuestra enmienda es más completa habla sobre lo mismo y complementa lo que usted plantea y proponemos que este parlamento rechace las inaceptables declaraciones de destacados representantes políticos

del pnv contra las actuaciones de la justicia en el caso de miguel declaraciones realizadas con el único y antidemocrático propósito de presionar y condicionar dichas

a los suyos para defender a los suyos y para desprestigiar a la justicia no hace falta ser un experto para

es evidente que es así se trata de desprestigiar a la justicia defender a los suyos y tratar de presionar a esa justicia por cierto declaraciones a las que otra vez la señora

o más bien turbias del partido nacionalista vasco como guardaespaldas de las esencias del partido nacionalista vasco o quizás más concretamente del señor

en declaraciones absolutamente inaceptables realizadas por dirigentes del partido nacionalista vasco y tiene el rostro de hacerlo en esta cámara absolutamente inaceptable

sus declaraciones demuestran que hay que votar a favor de la enmienda planteada por upyd o al menos tratar de llegar a un acuerdo a un texto común no pasa nada por ello

a la justicia acaban de presionar otra vez a la justicia para defender a los suyos en última instancia

y tampoco me parece que esté de más decir hoy aquí o exigir al gobierno

que mantengan que mantengamos un discurso contundente contra la lacra de la corrupción política el clientelismo y el amiguismo por qué no vamos a poder decir esto hoy que sobre todo tenemos que mantener un discurso contundente contra la corrupción política el amiguismo y el clientelismo

en la línea de lo que usted propone nuestro tercer punto complementa también lo que usted propone y lo mejora porque décimos que el gobierno presente

en la comisión correspondiente por lo tanto me parece que es una enmienda que complementa y que mejora la moción inicial vamos a ver señores del partido nacionalista vasco no es lo mismo decir por ejemplo respetamos las decisiones judiciales y queremos que se aclaren los hechos investigados

un representante del partido nacionalista vasco o de cualquier partido político un representante democrático y decente que el partido nacionalista vasco lleva cinco años maltratado escrutado y criticado por este tema o decir que hay una evidente manipulación y tergiversación para dañar la imagen

el interés de tirar piedras contra el tejado de euskadi no es lo mismo una cosa que la otra y de las dos maneras se puede defender la presunción de inocencia

la decisión de la justicia y que esos comportamientos en caso de ser ciertos son absolutamente inaceptables que atacar a la justicia no es lo mismo y esto lo entiende un niño de diez años señor lehendakari dígaselo a su portavoz parlamentario

en relación a esta cuestión dígaselo dígale que tiene que respetar las decisiones judiciales que tiene que decirlo que tiene que poner el acento en decir que respeta las decisiones judiciales y que esos comportamientos en caso de ser ciertos son absolutamente inaceptables dígaselo porque si no lo hace

ortuzar dígaselo por favor en fin para terminar visto lo visto

pero ya digo que me parece que es insuficiente y perdemos una oportunidad de oro para votar un texto mejor gracias eskerrik asko maneiro jauna

ha dicho el señor pastor extrañísimos casos que ha mencionado la señora arrizabalaga joe extrañísimos y que no tienen nada que ver con esto de lo que estamos hablando pues será que el señor pastor no se leyó en su día el dictamen de las conclusiones

porque estos casos extrañísimos de los que ha hablado eran la famosísima línea uno de investigación algo menos famosa pero muy trabajosa que ya tuvimos comparecencias al respecto segunda mitad de la línea cuatro de la comisión de investigación en uno sentencia absolutoria

las conclusiones y recomendaciones que recogen el dictamen y de las que estamos hablando hoy también se refieren ambos supuestos cuando dice el partido popular dice

insistencialista como el guadiana que aprendíamos en la escuela cuando teníamos no sé

y desaparece y lo digo casualmente aparece siempre en vísperas electorales es un insistencialismo

ese estado de derecho con el que se llena la boca muchas veces el partido popular con una interpretación

y otras formulaciones pero es que todavía creo recordar hace unos poquitos meses a la portavoz del gobierno

amparo al consejo general del poder judicial etcétera por un tema

comentó que le parece frívolo después de otro tipo de

de algunas declaraciones de representantes de nuestro partido que le parece frívolo no hacer ninguna referencia a la resolución judicial esa resolución judicial

en la justicia española porque tiene unos gráficos y que además tiene evidentes coincidencias morfológicas pero que se deben solo a que el dictamen parlamentario estuvo redactado por grandes exégetas del derecho bueno pues he cogido un pequeñito ejemplo un pequeñito ejemplo porque claro el auto de imputación es

son párrafos textuales sic o sea con letras con puntos con comas con mayúsculas y con minúsculas exactamente iguales que en el dictamen es un pequeño ejemplo no he querido traer más peso

copian el párrafo no sé quién copia a quién el párrafo está copiado este es el auto de imputación pero añaden una palabra que no estaba siquiera no estaba en el dictamen que aprobó este parlamento y esa palabra cuál es la pone el juez el parlamento no la puso

aquí se trata de algo muy sencillo nosotros no hemos establecido acusaciones contra nadie ni hemos hecho presunciones de culpabilidad hacia nadie hemos dicho una cosa muy sencilla que se cumpla el mandato parlamentario parece que es

es que es un error político de bulto lo que usted ha hecho en la primera intervención y en la segunda en la segunda ha dicho más o menos más o menos no lo ha dicho

connivencia entre determinados miembros de parlamento y determinados jueces para hacer una sentencia porque es lo que ha dicho usted aquí señalando el texto

se acuerda cuando el tribunal superior de justicia del país vasco abrió un juicio contra el lehendakari ibarretxe entonces

con comportamientos absolutamente distintos ustedes elevaron el tono pusieron el grito en el cielo convocaron manifestaciones ante los palacios de justicia paraguas en mano y nosotros que coincidíamos en gran parte con que nunca debiera de haberse abierto aquel juicio

independientemente de la valoración que nos pudiera merecer y aquellas actuaciones que eran de presión política y de intentar condicionar un resultado

dense cuenta ustedes yo entiendo que se sientan agredidos que estén dolidos y que quieran defenderse pero por favor

en este país eskerrik asko pastor jauna

en ningún momento he defendido ni la actuación del juez

ni he ido por ahí lo que he dicho es otra cosa que es que el caso de miguel si es un caso del partido nacionalista vasco al igual que son

intentan una y otra vez hacer la técnica de hacer un bárcenas han copiado

y ustedes lo que hacen es directamente se desvinculan políticamente de todo aquello que no tiene buen olor de su partido en cuanto les pillan ya no son personas de confianza del partido hasta entonces lo eran y mucho personas directamente de la estructura del partido ustedes esconden y se esconden de lo que es una forma de hacer política que es la suya

ustedes han hecho las leyes que les han permitido el amiguismo el clientelismo político

empresas pantallas mediante las cuales a través de ellas hay personas relacionadas de su partido

ustedes han creado ese sistema es suyo es suyo es propio del partido nacionalista vasco

si nosotros tenemos miedo a perder el poder o lo que sea no lo tenemos

lo que se demuestra es una cosa que enseguida les crecen los enanos

sobre las instituciones enseguida les crecen los enanos y salen como champiñones los casos de miguel los casos hiriko

que demuestran que su forma de hacer política que su forma de gestionar las instituciones no es tan buena no es ni tan honrada ni tan buena

mantienen a personas de su partido aprovechándose del dinero público de toda la ciudadanía y eso es lo que ha venido a ser mi tesis anterior para nada he venido a hacer
ninguna mención del auto del juez o sobre lo que dice el juez eskerrik asko

en definitiva de distribuir la carga fiscal de forma más justa y equitativa y para ello es fundamental trasladar la carga tributaria del trabajo y el consumo

de dichos bienes porque es injusto que la clase trabajadora aporte más del ochenta por ciento de la recaudación

menos de la mitad de la riqueza oinarrian bidegabea den banaketa ideologiko horrekin errotik aldatu beharrean gaude

horretatik doa para ello es necesario un impuesto real sobre la riqueza un impuesto no parcial y el impuesto sobre la riqueza

es la herramienta para este fin el impuesto sobre la riqueza y las grandes fortunas resumidamente afecta a aquellas personas con una riqueza superior a los setecientos mil euros

en vivienda habitual es un impuesto que promueve el uso productivo de la riqueza eliminando de una vez el mal llamado escudo fiscal y una cuestión fundamental es un impuesto

que aporta información sobre la riqueza de las personas una cuestión clave en la lucha contra el fraude fiscal puesto que las ganancias no declaradas todos sabemos que suelen acabar en bienes y este impuesto ayuda a descubrir esas incongruencias entre los que algunas personas dicen que ganan

que realmente atesoran se trata en definitiva de un impuesto clave para construir un sistema fiscal más justo y más progresivo

miren contra el impuesto sobre la riqueza y las grandes fortunas se han dicho y se dicen muchas mentiras se han retorcido los datos hasta la extenuación se han agitado miedos

vamos a volver a escuchar muchos de estos vistas las enmiendas presentadas

dos grupos que no han presentado enmienda alguna ya hemos oído en fechas recientes cómo el candidato del partido nacionalista a la diputación de gipuzkoa

en caso de que sea elegido será la eliminación del impuesto sobre la riqueza

es decir su prioridad es eliminar un impuesto que afecta al uno por ciento de la población y que supone

de la recaudación respecto al impuesto del patrimonio del ejercicio anterior está claro definitivamente quienes son la prioridad

en este caso enmienda ninguna por lo que le pedimos que mantenga su apoyo al impuesto sobre la riqueza y las grandes fortunas como ya hizo en gipuzkoa

y en la enmienda que nos ha presentado va más allá y aboga por una reducción general de los impuestos

marcada por un estado español que lo que de verdad ha rebajado casi hasta la eliminación son las políticas y los servicios públicos situando al estado con una tasa de paro por encima del veintitrés por ciento

con un veinte por ciento de la población bajo el umbral de la pobreza y con un once coma siete por ciento de la población que aun teniendo trabajo sigue siendo este sin duda no es el camino para el desarrollo de un estado del bienestar pleno upyd nos presenta una enmienda es casi igual a una moción que ya debatimos en este parlamento y ante la que todos los grupos ya nos posicionamos en aquel momento en contra

mucho más que añadir a la enmienda presentada por el grupo

muchas gracias señora presidenta la verdad es que hay que reconocerle a bildu que tiene valor para venir a plantear aquí

del país vasco pero le voy a decir solo un par de cosas perjudica al cien por ciento de los guipuzcoanos

y no beneficia a nadie y desde luego venir a decirnos aquí como nos ha dicho que gracias a este impuesto se salva el estado de bienestar social con una recaudación de veinte millónes de euros

con estos veinte millónes de euros que se han recaudado gracias a esta fantástica medida pues ya estamos todos salvados no hace falta hacer grandes cosas más yo podría estar de acuerdo solo con una cosa que usted ha dicho

como todos los impuestos de patrimonio sirve para conocer que es para lo que se creó en su día hace más de treinta años impuesto extraordinario que era para conocer

para eso servía no servía para y nunca fue la finalidad de ese impuesto la recaudación porque evidentemente no corrige desigualdades yo le voy por qué

y este impuesto existe en gipuzkoa porque aquí hubo un pacto fiscal entre partido socialista y partido nacionalista vasco

nos sumamos en parte para corregir algunas de las cosas que se planteaban

y beneficiar la creación de empleo y por qué no se armonizó esto en gipuzkoa

y es evidente que se van a enterar y que es esta es una medida como todas las medidas fiscales de este tipo

que tienen ustedes la diputación foral y la hacienda de gipuzkoa la manejan ustedes ustedes saben quiénes se han deslocalizado lo que no nos han dicho es

han dejado de ingresar y no me hable de expertos ustedes tienen los datos la haciendo foral expertos dicen expertos no esto no es un caso de expertos este es un caso de números de dinero

yo le voy a decir por qué es muy malo y además contradictorio con lo que usted dice porque dice que esto fomenta un uso productivo de la riqueza esta es la mayor falsedad de lo que se ha dicho hoy aquí de todo me dice no porque están exentos setecientos

un autónomo que tenga beneficios como se le ocurra reinvertir en la empresa para crear empleo van ustedes y lo crujen

ese empresario esa pequeña empresa si tiene beneficios lo mejor que puede hacer es no reinvertirlo porque entonces

impuesto de la riqueza sí esto es así entonces es mucho mejor que se lo gaste

en viajes por ejemplo porque eso no computa al año siguiente como impuesto de la riqueza

esta es la medida tan brillante que ustedes han planteado dice que no es confiscatorio

en su grupo no sé si todos pero usted sí sabe y usted sabe por qué estaba puesto el escudo fiscal y usted sabe por qué es confiscatorio y por qué no es confiscatorio usted conoce las sentencias del tribunal constitucional y todavía nos encontraremos

llega y en su momento declara que esto es anticonstitucional

habrá que devolver y cuál es la finalidad cuando se hace política con la fiscalidad y aquí últimamente

vamos a hacer esto van a pagar los ricos años llevo diciendo aquí que jamás he visto pagar a los ricos de verdad

siempre los mismos más usted dice que hay que beneficiar a las rentas más bajas bájeles el irpf a las rentas más bajas haga como mariano rajoy

vamos a beneficiar a las rentas más bajas por qué no hacen eso claro los que ganan hasta quince mil euros vamos a bajarles al diecinueve por ciento

y a las rentas obreras claro y a los asalariados

para nada a las rentas más bajas como usted dice a mí no me venga haciendo planteen ustedes la bajada de verdad de los tipos vamos a hacer la misma como lo he puesto en mi enmienda vamos a hacer lo mismo que se ha hecho en españa

que los que ganen menos de quince mil paguen por lo menos

si tanto le interesa y de verdad los defiende tanto háganlo

cuando se penaliza el ahorro se penaliza la inversión se perjudica el empleo

todo es que lo sabe usted también por eso ha hecho el discurso distinto de lo que de verdad de

cuando dice el uso productivo de la riqueza el uso productivo de la riqueza se hace precisamente con lo contrario oiga usted autónomo usted pequeño empresario reinvierte

le voy a bajar el impuesto eso es fomentar el uso productivo del ahorro

y lo contrario es perjudicarlo y esto es así de claro

le repito los culpables de esto no son ustedes esto hoy vigente en gipuzkoa porque estos señores y aquellos señores que por cierto estos señores y aquellos señores se negaron a trasladarlo a álava y a bizkaia y por qué está en gipuzkoa para que se enteren los guipuzcoanos de lo que votaron como se nos dijo a nosotros yo qué quiere que le diga

entonces que los guipuzcoanos quieren perjudicarse a sí mismo pues yo qué quiere que le diga libre son ellos votan

y ellos deciden lo que quieren hacer yo como vizcaíno evidentemente

me niego incluso me puede parecer hasta bien que contribuyentes

si fuera cántabro o de castilla o de la rioja yo le aprobaría su proposición

yo se la aprobaría porque lo que intentaría es que

pero como soy vizcaíno evidentemente le tengo que votar en contra

sí gracias presidenta vamos a votar en contra

creo que esta iniciativa de eh bildu plantea tres cuestiones distintas pero que son cuestiones que están relacionadas entre sí voy a hacer una reflexión general sobre todas ellas voy a señalar cuál es la posición de upyd

mi propuesta que evidentemente va a ser rechazada de la misma forma que ya se rechazó lo sé hace algunos meses en este parlamento pero creo que detrás de lo que plantea eh bildu se puede vislumbrar tres cuestiones diferentes pero que están todas ellas relacionadas creo que

se concluye que eh bildu quiere que de alguna forma este parlamento decida sobre la fiscalidad que afecta al conjunto de la ciudadanía vasca

creo que esto de hecho debería ser así creo que este parlamento debería decidir sobre la fiscalidad que afecta al conjunto de los ciudadanos no únicamente debatir o aconsejar o instar a las juntas generales de los territorios históricos que lleven a cabo una política fiscal u otra sino que creo que

decidir definitivamente la fiscalidad que afecta a los ciudadanos vascos creo que esto lo plantea eh bildu aunque ciertamente de manera indirecta nosotros con eso

es que sería bueno sería conveniente que el conjunto de los ciudadanos vascos tuviera el mismo impuesto de patrimonio y que por lo tanto el impuesto de patrimonio de gipuzkoa sea el mismo que el impuesto de patrimonio de bizkaia y que el impuesto

de álava es decir creo que eh bildu con esta iniciativa pone de alguna forma en valor la necesaria armonización fiscal creo que no defiende lo mismo para

para el conjunto de españa por ejemplo o no sé si para el conjunto de europa pero creo que está defendiendo la armonización fiscal y a nosotros esto también nos parece bien

y en tercer lugar lo que defiende eh bildu de manera digamos más clara es que el impuesto de patrimonio vigente en el conjunto de euskadi sea el que es hoy vigente en gipuzkoa nosotros esto no lo compartimos no lo apoyamos y no vamos a apoyarlo

a la necesidad de armonizar los impuestos de patrimonio y no hemos presentado ciertamente ninguna propuesta alternativa a este impuesto de patrimonio porque hubiera sido en vano no habría servido para nada habría sido rechazada por el resto de grupos y además los competentes a día de hoy son las juntas generales de los territorios históricos por lo tanto presentar un impuesto de patrimonio alternativo

cuál es el impuesto de patrimonio que habría que implantar en cada uno de los territorios históricos me parece simplemente una pérdida de tiempo se podría hacer pero no es lo que va a hacer upyd a día de hoy sí diré por cierto que no vamos a defender incrementos de impuestos mientras no se reduzca todo el gasto improductivo existente en euskadi tras la reforma fiscal pactada entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi reforma

nosotros no vamos a proponer nuevos incrementos fiscales mientras el inmenso gasto improductivo y superfluo que sigue existiendo en euskadi

mejorar la progresividad del impuesto sobre la renta de las personas físicas o que las rentas

del trabajo pero pensamos que tampoco es el debate de hoy en fin nosotros hemos presentado una enmienda que es muy semejante a la que ya defendimos aquí hace

por todos los grupos el punto uno considerar que euskadi precisa de un sistema tributario armonizado con una presión fiscal global equivalente para todos los ciudadanos de la comunidad

justicia y equidad esto ya se aprobó en su momento de hecho fue una propuesta del grupo socialista en aquel debate monográfico sobre fiscalidad en el punto dos lo que proponemos es un modelo para que

se ayude a armonizar los impuestos de patrimonio hoy vigentes fue un modelo que lo defendimos el pasado mes de noviembre y que no gustó al resto

criticable pero en todo caso lo que nosotros queremos poner en valor es la necesidad de armonizar ese impuesto de patrimonio y es la fórmula que nosotros planteamos seguramente haya mejores pero es la que defendimos en su momento y finalmente lo que proponemos es que este parlamento defienda la implantación de una sola política fiscal

reclama y se compromete él mismo a impulsar todos los cambios y todas las reformas legales que sean necesarias para alcanzar dicho objetivo y el cumplimiento en euskadi españa y europa de dos principios que consideramos absolutamente fundamentales igualdad fiscal e igualdad ciudadana queda mucho para alcanzar

objetivos indispensables los expertos en fiscalidad señalan que si hay un impuesto que aconseja estar armonizado para evitar deslocalizaciones

su domicilio fiscal esto lo sabemos todos e incluso

el partido socialista de euskadi y el partido popular se comprometieron a dar ese paso y a armonizar el único tributo que había quedado pendiente de armonizar después de la reforma fiscal sin embargo han pasado los meses e incluso algún año y todavía no se ha dado ningún paso en enero del año dos mil catorce se decía que

la armonización del impuesto de patrimonio en la agenda de dos mil catorce se ha hecho sobre la cuestión no interesa quizá o

el veintitrés de enero de dos mil catorce en un medio de comunicación se titulaba el partido nacionalista vasco mueve ficha para armonizar en euskadi el impuesto de patrimonio y cerrar el círculo tampoco se ha hecho nada en relación a esta cuestión en todo caso lo que nosotros queremos decir es que nos parece indispensable que el impuesto de patrimonio sea el mismo

y en álava es lo que defendemos con nuestra enmienda planteamos un modelo la creación de una ponencia

cuál es ese impuesto de la misma forma que lo planteamos hace algunos meses no gustó en aquel momento me imagino que hoy tampoco gusta

que hay que armonizar todos los impuestos y en concreto este impuesto que queda pendiente de ser armonizado como es el impuesto de patrimonio nada más y gracias eskerrik asko

presidenta señorías bildu nos plantea que hagamos una valoración

y que este parlamento lo haga suyo y lo traslade a las diputaciones forales de alava y de

yo quiero poner en antecedentes para señalar cuál es la posición del partido socialista en que momento

después de mucho tiempo intentándolo después de mucho tesón después de mucha insistencia el partido socialista consiguió que en esta cámara se

que era por primera vez en su historia desde su constitución hacer

y una posición política en profundidad sobre el papel de la fiscalidad de esta institución en relación al conjunto de la sociedad vasca esto ocurrió

del dos mil trece a finales del dos mil trece y después de un amplio debate de un debate transversal de un debate muy abierto de un debate se concluyó con un montón de resoluciones casi treinta o alrededor de treinta donde hubo además posiciones de acuerdo y alianzas

se acordaron una serie de resoluciones esas resoluciones pasaban porque este parlamento tomaba posición política sobre la fiscalidad en el país vasco

para que hicieran ese trabajo de colaboración y de armonización con este parlamento esto dio

dio pie a políticas de coordinación políticas de evaluación

de lucha contra el fraude fiscal a la comisión conjunta institucional para esa lucha contra el fraude fiscal

a coordinar y a trabajar más fácilmente sobre la conexión de datos fue un debate que

muchísimo peso muchísima importancia en el aspecto de la fiscalidad y que obviamente después había que ir desarrollando yo puedo convenir con quien así piense que algunas de aquellas resoluciones no han sido suficientemente trabajadas

contra el fraude fiscal nosotros hemos creído en nuestra iniciativas que las conocen todos ustedes

contra el fraude fiscal ser más eficaces establecer objetivos cuantificar medir que existiera un compromiso político mucho más

de las instituciones bueno no lo hemos conseguido porque luego cuando hemos planteado estas iniciativas hemos tenido algunas dificultades pero a trancas y barrancas también en ese aspecto

para que la lucha contra el fraude fiscal sea más eficaz en resumen diría que nosotros hicimos una propuesta de reforma fiscal

muy política muy de país muy de ver al país en su conjunto muy de provocar una política de igualdad en el conjunto de la sociedad vasca nuestras pretensiones no se lograron del todo avanzaron bastante pero obviamente hubo que someterlas a una mayoría que nosotros no tenemos y que por lo tanto necesita

empieza a dar resultados en muchas áreas una de ellas es en la capacidad de recaudar nosotros empezamos esta legislatura

en el que había que recortar los presupuestos de una forma tremenda y estamos en una situación diferente porque además ha habido un incremento de recursos

como consecuencia de esa reforma fiscal y también obviamente por la evolución de otras variables estamos por lo tanto en un momento

relativa prontitud para poder evaluar esa reforma fiscal y yo creo que no es bueno trufar esa reforma fiscal amplia que se hizo

es cierto que hay alguna diferencia de tributación en este caso en la del impuesto sobre la riqueza hay una

es cierto que una de las resoluciones planteaba esa harmonización planteaba que se revisara todo esto y que se viera qué había que hacer que no se ha hecho todavía el órgano correspondiente donde se reúne el gobierno y las diputaciones esto no se ha hecho o no se ha querido hacer o se ha dejado para otro momento es cierto que algunas cosas

esta pero lo que no podemos hacer es que una reforma fiscal importante como la que se hizo el año dos mil trece y que todavía tiene que dar frutos esté cada dos por tres

de iniciativas muy concretas que pueden tener un interés político yo no lo discuto yo creo que la iniciativa que plantea bildu es una iniciativa que tiene su interés político que tiene su interés en una determinada definición o modelo de sociedad en una forma de plantear una progresividad fiscal pero que no es el momento de hacer este planteamiento de forma común porque sería tanto como no haber evaluado no haber llevado a efecto adecuadamente la reforma fiscal que hicimos no haberla evaluado suficientemente no haber hecho un debate tranquilo sobre

cosa que todavía no está terminada introducir elementos

de aquella reforma fiscal que pretendió ser bastante completa la del año dos mil trece por lo tanto nosotros vamos a rechazar la propuesta que hace bildu lo que queremos es seguir desarrollando seguir profundizando seguir evaluando lo que ha sido la reforma fiscal del dos mil trece y en esta posición nos vamos a mantener no es la primera vez que lo hacemos

plantea algún tipo de reforma completa en este período

jaunak esan du que sus pretensiones no fueron satisfechas íntegramente

zuen jarrera da o es lo mío integramente

y no estoy de acuerdo con usted señor damborenea cuando dice que este impuesto no beneficia a nadie perjudica a todos y que no beneficia a nadie sí beneficia y le voy a poner un ejemplo

veinte millónes de euros en bienes ociosos no vinculados a ninguna actividad empresarial que por tanto ni generan empleo ni generan riqueza para el país veinte millónes en patrimonio ocioso y cinco millónes de euros vinculados a la actividad empresarial antes en gipuzkoa pagarían trescientos ochenta y dos mil doscientos eta badakizu

zenbat ordaintzen daben orain ahora en gipuzkoa pagan ciento noventa y cinco mil novecientos veinticinco euros

menos de lo que antes pagarían los que verdaderamente son ricos ricos y poniendo la carga sobre los pequeños los que tienen

que genera riqueza para el país y empleo hori da errealitatea horretaz aparte guk

egun on berriz ere ordenean joaten saiatuko naiz señor damborenea que usted y yo no estemos de acuerdo porque si usted y yo estamos de acuerdo en temas de estos pues mal andaríamos

porque al cien por ciento de los guipuzcoanos nunca va a perjudicar un impuesto y además insisto los impuestos

haga la aportación a la sociedad que le corresponde y en este caso las personas que más tienen tendrán que hacer un esfuerzo algo mayor

de a pie que hace otro tipo de impuestos y no perjudica al cien por ciento de los guipuzcoanos porque con ese incremento de recaudación se han podido realizar muchas labores y la diputación de gipuzkoa ha podido mantener

a favor de los guipuzcoanos y las guipuzcoanas que realmente lo necesitan

se la recojo sí lo conozco y que la finalidad no es la recaudación porque no consigue eliminar desigualdades

su último fin no es la recaudación es otro pero es que los impuestos no son individuales están dentro de un conjunto de un grupo y este impuesto tiene unas finalidades concretas y una de ellas es que aquellos que más tienen hagan ese plus de aportación que sí es recaudación pero evidentemente tiene otras finalidades como ya les he explicado en mi primera intervención y no voy a explicar porque si no

vamos mal de tiempo bueno que algunos le han dicho que este impuesto existe en gipuzkoa porque los guipuzcoanos se tienen que enterar de lo que han votado pues bueno

sabrá por qué hace política nosotros hacemos política no para que alguien

nosotros siempre hacemos política en beneficio de la ciudadanía y esa es la razón de este impuesto en gipuzkoa y en relación a las deslocalizaciones

evidentemente que hay datos y yo no tengo ningún problema en decirle los datos pero es que no hagamos una montaña de un grano de arena señor damborenea

y fueron cuarenta y nueve personas las que se fueron sí y entraron sesenta y uno y usted me dice no se han deslocalizado por el impuesto

que oh sorpresa no tiene impuesto de patrimonio qué es lo que me quiere indicar qué tenemos que quitar los impuestos de patrimonio qué tenemos que convertirnos en un paraíso fiscal

pues dígalo si ya sé que es lo que usted quiere estoy segura que es lo que usted quiere

pero para mí se lo aseguro que no se lo aseguro que no y evidentemente

qué pasa que porque otros no hagan tenemos que dejar de hacer pues por esa regla de tres en un mundo global donde existen los paraísos fiscales nunca haríamos nada en cuestiones fiscales nada cero porque siempre va a existir un paraíso fiscal donde los ricos vayan a poder ir porque hay poderes políticos económicos y lobbies

hacer desaparecer o por lo menos controlar y bueno que es falso que

sin un solo soporte nada absolutamente nada vuelta a decir lo mismo lo mismo y lo mismo la inversión productiva se fomenta se fomenta de una manera muy sencilla haciendo que la inversión productiva sea más rentable

y eso es así a upyd ya está todo dicho partido socialista y partido nacionalista vasco me han bajado los dos a hablar de su reforma fiscal pero muy poquito

que es un debate que hay que hacer que es un debate que hay que incarle el diente y ustedes

no han querido se han escudado en su gran reforma fiscal en que tal en que hay que hacer en que no hay que hacer y yo insisto al partido socialista ustedes apoyaron este impuesto y es que hace escasos meses en septiembre una representante del partido socialista en esta cámara en una comisión dijo es un hecho claramente constatado

y es que el modelo fiscal ahora mismo en gipuzkoa es el más eficiente y equitativo de los tres territorios de la comunidad autónoma vasca es una norma foral que beneficia a aquellos empresarios que utilizan su patrimonio empresarial

no tengo mucho más que decir lo ha dicho un representante del partido socialista en esta cámara hace escasos meses vuelvan a los principios y dejen

encima me habla otra vez de la armonización cuando en su momento aquí le rebatió al señor maneiro

de si existía o no existía y usted decía que existía la armonización por lo que bueno pues usted sabrá cuál es el argumento que quiere llevarnos

respecto al escudo fiscal mira esto es muy fácil dos personas que tienen el mismo valor de riqueza seis millónes de euros si uno de ellos son bienes y los alquila

lo mismo seis millónes de euros en pisos que no los mueve no paga irpf y no paga patrimonio eso es así y

bakarrik bukatzeko aquí no han querido el debate no han querido hablar del impuesto y se han

en una reforma fiscal que ustedes saben que se quedo corta y muy corta eskerrik asko pinedo andrea euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

muchas gracias señora presidenta señor maneiro el partido popular sí planteó en las juntas de gipuzkoa

con escaso éxito como evidentemente se demostró y por eso tenemos este debate aquí si no no lo tendríamos sería de otra forma y con escaso éxito

que sigue vigente en gipuzkoa pese a que partido socialista partido nacionalista vasco y partido popular tenían mayoría hiper absoluta y se votó en contra por quienes se votó en contra por lo tanto señor prieto no diga que es que no se ha armonizado en la la desarmonización que hay es la que

y luego gracias al pacto que hicieron con el partido nacionalista vasco para que eso no se tocara

que su gran candidato se queja de este impuesto en gipuzkoa pues yo ya no entiendo nada

prefirió que fuera bildu quien llevara la diputación de gipuzkoa claro es que cuando ustedes pactaron la reforma fiscal con aquellos señores

esto esto quedo fuera por lo tanto

los culpables son estos señores bueno estos señores querían eso pero lo han podido hacer gracias a ustedes durante cuatro años

a salvar a no sé quien de lo que ustedes han permitido que se haga esto es lo que queda un poco raro hoy en el dos mil quince

claro nos dice la representante de bildu que los impuestos no perjudican hombre

y al fomento del empleo me dice usted la finalidad es la información

pues para eso no hace falta que las inversiones se contabilicen si la finalidad de este impuesto era la información

la finalidad de esto no era la información y usted lo sabe fue hacer demagogia fiscal que queda muy bien pero luego sí hay perjuicios pero los perjuicios se van viendo claro me dice usted la mayoría se han ido a madrid que no hay impuesto de patrimonio y entonces ahora madrid resulta que es un paraíso fiscal hace poco

teníamos los impuestos más altos de toda europa y ahora resulta que es un paraíso fiscal

recauda más de verdad con esos contribuyentes la diputación de gipuzkoa hoy o recaudaba más antes con esos mismos

y les hacen pagan este impuesto pero esos que verdad tenían dinero y se han ido

y en patrimonio la diputación de gipuzkoa y cuanto ingresa ahora con esos nuevos que usted dice

de que alguien con seis millónes de euros me da igual si es en pisos o no sé qué que no declaren impuesto de patrimonio

claro que paga en las tres provincias no sé de donde se ha sacado eso de que si tienes seis millónes de euros en pisos no paga impuesto de patrimonio

por lo menos hasta donde yo sé salvo que en gipuzkoa tengan alguna norma de estas que no conozcamos

con la diputación pero vamos me extrañaría que estén de verdad en eso ahora si de verdad les interesa a todos las rentas más bajas los trabajadores asalariados etcétera etcétera les repito si les interesa de verdad esos vamos a bajarles el tipo del irpf a los que ganan menos de quince mil euros vamos a poner como en el resto de españa al diecinueve por ciento

pero por qué nunca y siempre se niegan a rebajarles los impuestos sabe por qué sabe por qué y da igual que este bildu o el pnv o el psoe de diputados de hacienda sabe por qué ocurre porque al final en el tramo de cero a cuarenta mil euros

y entonces ningún diputado de hacienda quiere rebajar a los que menos ganan porque al final es de donde de verdad se recauda

los trabajadores los asalariados rebájenles a esos

dos cosas la primera el relato de los hechos para que no se hagan planteamientos equivocados en el año dos mil doce se hizo una reforma fiscal en gipuzkoa a consecuencia de esa reforma fiscal que se hizo en gipuzkoa

este impuesto de la riqueza donde efectivamente el partido socialista estuvo de acuerdo esta

que se llevo en gipuzkoa cuando era imposible llevarla a nivel general en el país vasco como nosotros veníamos insistiendo porque no conseguíamos una mayoría en este parlamento

nacionalista vasco rechazaron nuestras propuestas nuestras iniciativas para hacer una reforma fiscal global en el país vasco y hubo que esperar insistiendo no pasivamente sino activamente como hicimos los socialistas

políticas de necesidad de otras correlaciones de fuerzas para que

presupuestarios acuerdos de empleo acuerdos institucionales se produjera también un acuerdo de fiscalidad y esto es lo que hizo traer aquí el debate de fiscalidad el partido socialista venía desde hacía mucho tiempo

lo intentamos lo propusimos muchas veces cuando el lehendakari

en muchas ocasiones y no hubo forma no se daban esas mayorías y por lo tanto mientras esto ocurría en la política en gipuzkoa se generaban

el impuesto de la riqueza bueno cuando después en el año dos mil trece se llega a un acuerdo político y ese acuerdo político tiene un embrión con el partido nacionalista vasco y después se abre porque es un acuerdo transversal y tiene la aportación y el apoyo de muchos y de forma

que es la que se consigue acordar que no es la que quiere el partido socialista que seguramente tampoco era la que quería el partido nacionalista vasco ni la que quería el partido popular ni la que quería bildu que también ustedes ustedes nosotros

porque estábamos de acuerdo con las resoluciones nosotros no estábamos en contra de que pudiera haber un tratamiento similar al de gipuzkoa en el impuesto de la riqueza

ese fue uno de los muchos asuntos que se tuvo que aparcar entre las propuestas que cada uno fuimos haciendo

tenemos una propuesta fiscal que es la del dos mil trece que como he dicho antes necesita todavía recorrido que hay que desarrollarla mucho más que hay que evaluarla y que después sobre ella hay que ver si hay que plantear algunas modificaciones señora pinedo la señora corcuera en todo caso cuando hizo aquellas manifestaciones que usted no la ha citado a ella pero ha leído aquí

cuando hace aquellas manifestaciones en todo caso el comentario que creo que correspondía que hubiera hecho usted

a la consejera tapia cuando hizo una afirmación de que los empresarios de gipuzkoa se iban marchando porque

esta significaba un gravamen insoportable para esos empresarios cuando hizo

a esta fiscalidad guipuzcoana y cuando además dijo que esto dañaba a los empresarios guipuzcoanos

en todos los sitios y también en gipuzkoa lo que hizo fue salir en defensa de esa reforma fiscal que por cierto esa como fue en una comisión de desarrollo económico quizás a quien le hubiera tocado hacer esa defensa no hubiera sido la señora corcuera sino a algún representante de bildu en la comisión por lo tanto se podría haber citado así mismo si usted la hizo no hacía falta que citara a nadie más como lo que abunda no daña se suele decir pues mire también hubo esa afirmación favorable

y por último señor damborenea nosotros no un acuerdo para desarmonizar absolutamente nada sino todo lo contrario hicimos un acuerdo para armonizar se armoniza hasta donde las sumas dan

y para conseguir que aquí se aprueben las resoluciones y obviamente este impuesto de la riqueza no pudo ser tratado en más profundidad como también nos hubiera gustado a nosotros porque no había esa suma y esos apoyos en cualquier caso para nosotros los impuestos

una carga para nosotros los impuestos no son un gravamen para la ciudadanía sino que los impuestos son una forma de hacer política para procurar servicios políticas sociales inversiones oportunidades para los ciudadanos y por lo tanto para que haya una intervención pública yo entiendo que

que no es de apoyo a la intervención pública porque no es de apoyo a las políticas de igualdad usted tire contra todo pero en fin cada uno tiene su filosofía política la nuestra es clara es evidente estamos a favor de una participación creciente de lo público para que haya unas políticas de mayor redistribución y de mayor igualdad y desde ahí hemos venido defendiendo siempre nuestras posiciones políticas hemos sacado adelante aquellas para las que hemos tenido suma para las que no hemos tenido suma

sin miedo a quedarnos calvo se acuerda pues entonces no diga que el partido nacionalista vasco cambia de posición

no ahora porque estemos en elecciones siempre pero tenemos que negociar tenemos que pactar y hay que avanzar y eso es lo que nos caracteriza cintura claro señor damborenea

no décimos claro cuál es nuestra posición en relación con este impuesto lo décimos y bien clara bien clara

que este país necesita estabilidad que este país necesita acuerdos y que para eso estamos dispuestos señor damborenea

sin tener miedo a quedarnos calvas y calvos le vuelvo a decir por cierto en cuanto a lo de bajar los impuestos mire yo lo que le diría iría a madrid

y dígales que sigan bajando que todavía tienen margen que sigan bajando y que todavía tengan margen que se tomen este tema con más seriedad y con más rigor y con menos populismo que bajen por ejemplo el impuesto y el tratamiento de las indemnizaciones por despido usted habla de las personas más desfavorecidas pues por ejemplo también que sea deducible el alquiler por vivienda habitual eso es ayudar a la personas con menos recursos y ustedes

no tienen deducción por este concepto por poner algunos ejemplos que se me han ocurrido ahora

derrigorrez lurralde historikoetako presio fiskalak baliokideak ez direnik podemos concluir que el mero hecho de que

que las presiones fiscales de los distintos territorios históricos no sean equivalentes